no funciona esto voto como el resto de mi grupo que no funciona

lo mismo no consigo activar el voto afirmativo berriro probatuko dugu

que hoy presentamos se ajusta perfectamente a los propósitos y objetivos que acabo de exponer consta de un título preliminar en el que fundamentalmente se delimita el objetivo de la ley

básicos sus fines y se definen las características y las personas destinatarias el título primero trata de los

los ámbitos y programas de formación se potencia la formación a distancia

mayores dificultades de acceso a esa formación y por eso y para eso se crea el instituto vasco de formación a distancia

los distintos centros del departamento de educación dedicados a impartir enseñanza en esta modalidad el título segundo desarrolla los principios del sistema integrado de formación profesional y regula y esto es importante el dispositivo de evaluación y acreditación de las competencias

a través de la experiencia laboral regula asimismo los centros integrados de formación profesional y coordina las competencias de los departamentos competentes en educación y en empleo el título tercero establece la base del servicio integrado de orientación a lo largo de la vida

como órgano de planificación y coordinación de las distintas iniciativas en este campo

perfecta coherencia entre los objetivos propuestos y los medios definidos para alcanzarlos euskadi señorías no tiene una ley de aprendizaje

y esta es la ocasión para dotarnos de un instrumento legal e imprescindible para la educación vasca del siglo veintiuno el conjunto de cambios e incesantes propios de una sociedad del conocimiento que avanza a ritmos acelerados y de una economía globalizada nos obliga a una atención educativa permanente que ha de extenderse sin duda a lo largo de la vida nos demanda un nuevo de la educación y la formación que aborde los nuevos desafíos de la sociedad del conocimiento y facilite a nuestros conciudadanos y conciudadanas su desarrollo personal social y laboral aspectos

unidos entre sí por todo ello señorías les pido su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley de aprendizaje
a lo largo de la vida muchas gracias y nada más eskerrik asko

desde el escaño para fijar posición favorable a la tramitación de la proposición de ley señora celaá ya habrá tiempo y tendremos oportunidad de discutir y de debatir sobre el fondo como ya se hizo por cierto

con el concurso decidido del partido popular como será también en esta votaremos a favor señora presidenta

expresados por la señora celaá y porque es verdad también que existe un

que coordinado con otras instituciones y con comunidades autónomas con esta proposición de ley que hoy

y dotamos a euskadi de una herramienta muy interesante también y muy importante para

tantas decenas de miles de ciudadanos vascos por lo tanto gracias señora presidenta eskerrik asko semper jauna

honek automatikoki baztertu egiten ditu balizko ikasle guztiak desaparece el trabajo que hay que realizar para traer al sistema

si las personas destinatarias son las que ya han dado el paso de emprender pierde sentido todo el sistema de orientación y toda la filosofía de atraer a cada vez más personas al aprendizaje por eso nos entra la sospecha esta ley es para la formación profesional con un disfraz

los objetivos de la ley se empiezan a comprender al analizar la proliferación de organismos que se crean y se proponen sobre los cuales hubiera sido necesario contar con un análisis de impacto cuestión que no se ha realizado formación a distancia consejo vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que vistas sus funciones no es más que un intento de modificación de lo que es el consejo

buenos días señoras y señores consejeros lehendakari nosotros estamos bastante de acuerdo con algunas o bastantes de las cosas que ha planteado el grupo proponente

propuesta inicial como en los planteamientos que ha realizado la portavoz del grupo proponente y estamos de acuerdo con que se inste al gobierno vasco que lo mejor en estos momentos es paralizar los proyectos y obras

atravesando el barrio de el antiguo y estamos de acuerdo también en que se inste al gobierno vasco a que impulse aquellos proyectos que respondan

de los ciudadanos y que potencie la intermodalidad y que mejore el transporte público

a esto a lo que se debería dedicar prioritariamente el gobierno vasco actual creo también que por las declaraciones que ha venido realizando la consejera creo que está bastante mentalizada en que este gobierno debe dedicarse prioritariamente a ello por lo tanto nosotros no nos duele en prendas en decir que estamos bastante de acuerdo

ha venido diciendo en las últimas semanas no con todo pero sí con muchas de esas cosas que ha venido diciendo

haciendo la consejera del gobierno vasco

un discurso razonable y nosotros efectivamente nos alegramos de ello en fin ya digo estamos de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho en las últimas semanas la

para proyectos faraónicos o cuando decía la consejera que en el actual escenario no se puede seguir adelante con la pasante lugaritz la concha

o cuando la consejera apostó por los mejora de la red ferroviaria de cercanías para toda la zona de donostialdea es decir de la parte conocida como topo

declaraciones las compartimos y las apoyamos o cuando decía también que no estamos en condiciones de podernos permitir esa pasante y no solo por aspectos económicos sino también por cuestiones como la no disponibilidad de terreno y la falta de autorizaciones pertinentes en materia de costas o cuando desde fuentes de las consejería se decía que

creo que es un discurso bastante razonable teniendo en cuenta la situación actual por lo tanto compartimos ese discurso

incluso más que lo que pueden compartir algunos representantes del propio partido nacionalista vasco

compartimos en general ese discurso que ha venido realizando

tenía como intención mejorar como suele ser en estos casos la propuesta inicial y nosotros por eso proponíamos que este parlamento vasco inste al gobierno vasco

entre la estación de easo y el barrio de el antiguo por ser un proyecto que no está justificado ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico no es urgente y no

por eso decíamos y proponíamos que este parlamento debería instar al gobierno vasco a hacer un uso razonable responsable y sensato de los dineros públicos a abandonar proyectos de grandes infraestructuras que carecen

a tener en cuenta la situación económica y las estrecheces presupuestarias en la que nos encontramos y a priorizar la atención de las necesidades

nosotros proponíamos que este parlamento dijera también que el gobierno vasco lo que debe hacer es velar en todo caso por el interés general de los ciudadanos superando enfrentamientos territoriales superando discursos localistas superando localismos superando regionalismos nacionalismos creo que esto es lo que debería decir este parlamento y a lo que debería instar este parlamento al gobierno vasco y finalmente lo que proponíamos es que este parlamento vasco instara al gobierno vasco y al resto de instituciones a que todos los proyectos de inversión pública vayan acompañados por un estudio técnico competente riguroso

realmente una rentabilidad económica futura y o una rentabilidad económica social contrastable en fin yo no niego que determinados proyectos puedan ser calificados como ambiciosos o incluso

para poder prestar un determinado servicio a los ciudadanos tampoco niego tampoco negamos que el gobierno anterior o que el anterior consejero el señor arriola pusiera todo su empeño en su momento para tratar de hacer posible algo que él consideraba en ese momento factible necesario o incluso estratégico lo que nosotros planteamos es que tal como parece que ha planteado la consejera

es posible nosotros estamos seguros de ello que no se dan las circunstancias para poder llevarlo a cabo y por lo tanto si efectivamente no se dan las circunstancias para poder llevarlo a cabo

es decirlo y obrar en consecuencia otra vez hay que recordar parece mentira la situación de crisis económica en la que nos encontramos otra vez hay que recordar

otra vez parece mentira hay que recordar los ajustes que se avecinan

otra vez hay que volver a recordar parece mentira que este gobierno lo que debe hacer sobre todo es priorizar perfectamente el gasto y las inversiones que deben realizarse desechando todo aquello que no sea imprescindible en el momento actual porque las preguntas que debemos hacernos de dónde quitamos para hacer esto y esto es lo que deberían respondernos los grupos políticos que todavía apoyan este tipo de infraestructuras de dónde quitamos qué dejamos de hacer para hacer esto yo creo que esto es en definitiva la cuestión esencial y en todo caso

hacer todos sin excepción gobierno grupos políticos parlamentarios lo que deberíamos hacer cuanto antes de una vez por todas es superar el provincialismo y superar las luchas territoriales sin que esto implique tampoco tener solo en cuenta criterios poblacionales

las infraestructuras pero creo que es primordial superar de una vez por todas localismos y discursos localistas sí que deberíamos ser capaces de aceptar

obras no parece que tengan sentido por lo que he dicho antes los recursos son escasos y por lo tanto hay que hacer un uso riguroso de los dineros públicos en fin yo no sé si calificar a esta obra como obra faraónica desde luego

sin ningún tipo de dudas es el soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por vitoria y desde luego obra faraónica es el puerto exterior de pasajes pero sí que

que el enlace del barrio de el antiguo con la estación de easo por lo menos

y desde luego en estos momentos no es en absoluto prioritario y puede esperar porque realmente debe esperar porque no hay dinero suficiente para hacerlo en la situación actual

no se puede seguir adelante con la pasante y nosotros lo compartimos creo que es un hecho cierto que efectivamente no se puede seguir adelante con este proyecto y coincido con ella en que ahora lo más razonable

de donostialdea creo que durante demasiados años hemos estado en manos de políticos manirrotos e irresponsables que no hacían un uso responsable de los dineros públicos yo creo que esa época debemos dejarla atrás cuanto antes en españa ha sido algo habitual en fin gracias a determinados

a determinados políticos locales a determinadas políticas localistas a visiones localistas a irresponsabilidades varias y también a la ausencia de una política nacional hemos tenido

peatonales y tramos del tren de alta velocidad sin pasajeros cuando no obras faraónicas otro tipo de obras faraónicas como pueden ser faraónicas

bibliotecas vacías o rotondas millónarias sin coches esa es la realidad de la españa de los últimos años todo esto es lo que nos han llevado

irresponsables y creo que a partir de ahora hay que actuar de otro modo creo que la crisis económica debería al menos ayudar a determinados responsables políticos a que es prioritario siempre y ahora más hacer un uso razonable de los dineros públicos por lo tanto esa es nuestra posición está reflejada perfectamente en la enmienda de totalidad que presentamos

en cualquier caso y al partido nacionalista vasco le diría que

es de sabios creo que el grupo nacionalistas vascos ha corregido su posición inicial corregir es de sabios y por lo tanto yo debo decirles que eso

por lo tanto esa es la posición de upyd como digo nosotros votaremos nuestra enmienda de totalidad nada más y gracias presidenta eskerrik asko maneiro jauna euskal talde sozialistaren

de orden algo más que terminológico el proyecto del que estamos hablando no es el metro de san sebastián

metro donostialdea que es una solución de transporte interurbano

a una parte sustancial del territorio de gipuzkoa porque como ustedes saben el metro de donostialdea comprende además de donostia san sebastián municipios

conjunto de términos municipales que suponen aproximadamente un sesenta y cinco por ciento de la población de gipuzkoa y con la posibilidad además de conectar mediante un intercambiador en riberas de loiola con la red de cercanías de renfe lo que haría accesible a esta infraestructura

es un proyecto que ha contado con un amplio grado de consenso interinstitucional tanto a nivel municipal como a nivel de gipuzkoa y en este mismo parlamento vasco

aprobó con diecinueve votos a favor incluyendo los votos del partido socialista partido popular y partido nacionalista vasco una declaración institucional

también las juntas generales de gipuzkoa de forma reiterada han manifestado su apuesta por esta infraestructura y este propio parlamento acordó por una mayoría de setenta votos a favor instar al gobierno vasco a declarar estratégico

también hay que decir que ni en el trámite de audiencia de aprobación de la modificación

territorial sectorial de la red ferroviaria de la comunidad autónoma del país vasco relativa a la ordenación ferroviaria y al territorio histórico de guipúzcoa y en el estudio formativo del metro donostialdea el ayuntamiento donostia san sebastián

en contra de esta infraestructura los socialistas consideramos que

al igual que otras infraestructuras de transporte de su mismo rango

de ciudadanos y ciudadanas por eso no consideramos que las coyunturas políticas del momento ni siquiera las económicas deban resultar determinantes a la hora de concebir estos proyectos y dar los para su desarrollo si bien podemos entender que a la velocidad los ritmos y los plazos puedan adaptarse a la coyuntura económica y política compartimos

y de rentabilidad social y económica y en consecuencia la prioridad en inversión debe de ser aquellas soluciones

y mejoren el servicio ferroviario con una relación sostenible entre coste y beneficio ya que son estas inversiones las que van a asegurar la sostenibilidad y viabilidad futura al servicio además de permitir la mejora de la gestión

son condiciones y requisitos que cumple objetivamente el proyecto de metro donostialdea este proyecto entre otras cosas permite unificar a través de una pasante soterrada por donostia san sebastián la red propia de euskotren enlazando los dos extremos

el que viene del este el topo y el que viene del oeste línea bilbao san sebastián de tal manera que se elimina la estación del fondo de saco que constituye el actual estación de easo

esto redundará en un incremento exponencial de usuarios teniendo en cuenta que el trazado entre lasarte e irun siendo ya a día de hoy el tramo mayor número de usuarios

tiene un importantísimo potencial de crecimiento si las cosas se hacen bien

este planteamiento unió al desdoblamiento de líneas y otras inversiones en estaciones intercambiador de riberas etcétera hacen del metro donostialdea la operación más importante de gipuzkoa en el ámbito de transporte y movilidad

con la de renfe cercanías mediante el intercambiador de riberas de loyola lo cual haría posible que los usuarios que vienen desde el oeste puedan

conecten con la red de euskotren en este sentido este proyecto guarda muchas similitudes con el desarrollo de metro bilbao el cual como ustedes saben se construyó también a partir de la antigua red de euskotren

lo que hace posible un cambio sustancial en la movilidad de gipuzkoa y en su vertebración territorial y social ya que el proyecto transciende de una mera actuación ferroviaria que constituye un instrumento de importancia estratégica para el territorio la diputación de gipuzkoa así lo entendió la pasada legislatura

que plasmaba la voluntad de impulsar esta importante infraestructura

insisto en que este proyecto supone una revolución en la movilidad guipuzcoana pero además una revolución realmente sostenible

en base al estudio de viabilidad de metro donostialdea el ahorro de costes externos en esta infraestructura es muy importante y permite además lograr una movilidad más equilibrada dentro de los costes externos hay que tener en cuenta aspectos como el de la seguridad el de la contaminación

asimismo esta infraestructura propiciaría un ahorro de consumo de combustibles de treinta y ocho millónes de euros y supondría un ahorro importantísimo la emisión de gases de efecto invernadero por otra parte tenemos el ejemplo que supuso el metro de bilbao en su área metropolitana en términos de movilidad y crecimiento de transporte público ganando terreno al vehículo privado

realizados dentro del gran bilbao se han reducido del setenta y tres por ciento del total de los mismos al cuarenta y nueve por ciento

de donostialdea el uso del coche pasaría del sesenta y seis al cincuenta por ciento

el uso del vehículo privado a favor del transporte público desde el punto de vista de la captación de nuevos usuarios señalar que el estudio de viabilidad del método donostialdea

propiciando un incremento de veintiséis millónes es decir un cuatrocientos setenta por ciento de incremento pero para alcanzar este objetivo

la clave fundamental es la ejecución de la pasante

si la pasante no se ejecuta el resto de inversiones previstas en el ámbito de donostialdea no serán más que mejoras puntuales de la red con una capacidad muy limitada de captación

la actuación con mayores ratios de rentabilidad económico social y financiera

al transporte público ferroviario con un coste estimado de ciento ochenta millónes de euros cumpliendo

es la inversión en infraestructura de transporte más sostenible desde el punto de vista económico social con un ratio de nueve euros de coste e inversión por usuario pero el más bajo de todas las inversiones que se están acometiendo en euskadi

ferroviaria los tramos de la obra civil de la pasante soterrada

están adjudicados por un valor de noventa millónes de euros y existen créditos de compromiso hasta el dos mil dieciséis

por valor de ciento diez millónes de euros a los que hay que sumar cuarenta millónes de euros en créditos comprometidos hasta dos mil quince

la apuesta en servicio del metro donostialdea supondría además acabar con el déficit de explotación de euskotren en las vías zumaia donostia y lasarte hendaia en el año dos mil diecinueve

llegando en dos mil treinta a un coeficiente de cobertura de ciento veinte por ciento

readecuación de la actual oferta de transporte público una

y que permitiría optimizar recursos lo que a su vez facilitaría una mejor cobertura del transporte público de otras zonas de ámbito urbano o interurbano en definitiva la puesta en marcha del servicio

permite mejorar la vertebración territorial y social del corredor considerado

de una gran área metropolitana donde la movilidad entre los distintos municipios será accesible y de calidad para toda la ciudadanía con ello

articulada a través de un sistema de transporte fiable y de calidad según el estudio de viabilidad junto al estudio informativo el treinta y cinco coma sesenta y uno por ciento de los desplazamientos realizados en los servicios ferroviarios de euskotren se hacen por motivos de trabajo

esto demuestra que la puesta en servicio del metro donostialdea supondría un instrumento útil y eficaz

y para los estudiantes en sus desplazamientos del día a día por todo ello creemos honestamente y podemos calificar el metro donostialdea

por el tren social la apuesta por el tren de la gente por el tren que mejora el día a día de las personas

es un proyecto estratégico para gipuzkoa en términos de movilidad sostenible viabilidad económica y utilidad social

piénselo bien no cometan el error histórico

egun on guztioi me van a permitir que

la política en general pero especialmente la política vasca es de frases hechas de mucha cursilería si me lo permiten terminaba el señor maneiro diciendo que corregir es de sabios es de sabios cuando se corrige para bien

tiene sentido cuando el contenido que abarcan lo tiene y la corrección es buena pero cuando se corrige en positivo y también la política vasca a mí me suena demasiadas veces y ustedes que son gente ilustrada

el día de la marmota repetimos y repetimos debates hasta el fin de los tiempos en materia e infraestructuras y si encima ponemos el foco en gipuzkoa ni les cuento es el día de la marmota coja porque efectivamente no terminamos de cerrar debates y de tomar decisiones y es que no sé por qué qué especie de maldición divina nos ha caído a los guipuzcoanos

bien sean infraestructuras o fundamentalmente y me centraré en infraestructuras no se cierran nunca y todo genera problemas en gipuzkoa

no hay que hacer guipuzcoanismo no hay que hacer localismos bueno bien pero habrá que poner en valor al menos y habrá que poner el acento y habrá que reconocer insisto

siempre acaba en problemas y sobre todo

y no hablo de coste económico todo cuesta mucho en gipuzkoa pero no hablo de coste económico lo que nos cuesta es ponernos de acuerdo

y nos cuesta desbloquear problemas en euskadi en general pero en gipuzkoa en particular y claro al lógico debate y en contraste de infraestructuras de estas características debe de tener sino seríamos unos irresponsables si no hubiera debate

y si no hubiera enfrentamiento de modelos a ese lógico debate y en este caso se ha hecho

infraestructura se suma la indefinición la incapacidad se suma el complejo y también la falta de interés

que sempiternamente tenemos que padecer los guipuzcoanos porque

los argumentos de más peso son los de carácter presupuestario

hoy son los económicos porque sabemos que el pisuerga pasa por valladolid y que tenemos una crisis económica brutal

cualquiera lo puede identificar cualquier ciudadano efectivamente con determinados argumentos

puede sentirse identificado pero es que ese no es el problema vamos a hablar con claridad ni es un proyecto faraónico

ni es un proyecto desproporcionado económicamente ni es un gasto excesivo porque antes

los argumentos eran otros hoy son los económicos y antes eran otros comparto con la señora

estamos al final confrontando modelos no es solo una cuestión económica efectivamente que también y lógicamente cualquier gestos público debe de tener la variable económica sobre la mesa a la hora de tomar decisiones efectivamente pero no estamos hablando

de modelo de equilibrio territorial efectivamente de modelos de trasporte público

y aquí hay varios modelos contra puestos y es bueno que se pongan sobre la mesa miren

el gobierno vasco el que habla de un estudio de penetración con perdón del ferrocarril

después en el año mil novecientos noventa y siete el partido popular propone construir un metro subterráneo

alababa entonces el buen humor del partido popular por la propuesta del metro un ejemplo señor maneiro de corrección positiva el ayuntamiento luego en el año dos mil

les recuerdo que estamos en el año dos mil trece en el año dos mil también un estudio considera factible ampliar el topo a los barrios de donostia podríamos seguir pero en el año mil novecientos ochenta y nueve volviendo otra vez al origen de los tiempos

compartió también con un estudio para ver si existía esa posibilidad en san sebastián

miremos hoy el transporte público en bilbao en el área metropolitana del gran bilbao y miremos hoy el transporte público

guipuzcoanismo localismos la realidad el metro en bilbao

presupuestado en trescientos mil millónes de pesetas entonces y el de donostialdea

millónes de pesetas una rentabilidad social así planteado en los estudios

de cien abarcando a cien millónes de usuarios el de bilbao y de cincuenta

el de san sebastían mucho localismo y mucho guipuzcoanismo efectivamente miremos la realidad

a lo que hoy supone el transporte público en gipuzkoa en donostialdea

dos mil trece menos mal o que pena que no hubo más guipuzcoanismo pues bien

y así todo señorías y así funciona este país lo cierto al final la realidad es que la modernización

orden es una inversión útil y justificada para san sebastían

la piedra angular de este proyecto no es un proyecto no es una infraestructura para que alguien que vive en el antiguo vaya al casco viejo

gipuzkoa para darle un sentido al transporte público guipuzcoano y la construcción

efectivamente supondría una auténtica revolución en positivo para el transporte público en gipuzkoa una auténtica revolución que solo teniendo unas gafas de madera así de grandes no se puede ver

de la ciudad y es que conectaría donostialdea con el centro de la capital claro que sí y daría un servicio y ágil a cientos de miles de ciudadanos y el problema

es que el problema no es el metro señora arriola nos tenemos que dar cuenta de esto ya definitivamente el problema no es el metro ni es

el problema es que es san sebastían el problema que es es en gipuzkoa y se equivocan de verdad que se equivocan profundamente persistiendo

es un medio de transporte que beneficiaría al ochenta por ciento de la población guipuzcoana

de verdad pregunten no solo a los comerciantes de san sebastían

pregunten a los jóvenes que no pueden acceder a comprarse por ejemplo una vivienda en la carísima capital

con la capital pregunten pregunte por qué

a san sebastían y la realidad también

hoy eh bildu puede estar muy satisfecho puede estar muy satisfecho

en el partido nacionalista vasco y yo les tengo que reconocer que desde la sorpresa inicial al oír las palabras de las señora consejera

hoy estoy en la inmensa sorpresa viendo la transacción firmada entre el partido nacionalista vasco con bildu en gipuzkoa

y en el parlamento vasco tienen otro y creo que esta nueva alianza de parálisis guipuzcoana entre bildu

no sé si a ustedes les reportará algún tipo de beneficio pero desde luego lo que sé es que para gipuzkoa es una losa y es un lastre

localista o lo que sea lo que sé es que es un discurso que defiende los intereses de vascos que los guipuzcoanos también somos vascos

en gipuzkoa representados por eh bildu se suma el discurso de los subdelegados del gobierno de bilbao en gipuzkoa representados por el partido nacionalista

han conseguido ustedes paralizar una infraestructura fundamental y vital para el desarrollo y competitividad de gipuzkoa enhorabuena

mucho emplazamiento público llamando a la cofinanciación del proyecto y poco más

el señor arriola más de una vez nos ha criticado en poner en duda lo que se llamaba la pasante ferroviaria de donostia teniendo en cuenta que este llamado metro donosiataldea en este caso en la pasante ferroviaria era la inversión del departamento

tanto en proyectos pero sobre todo más dinero público dilapidó en propaganda

eso también lo denunciamos en esta cámara tanto incluso que como he dicho antes el parlamento denunció el uso partidista y electoral que el gobierno socialista estaba haciendo del mismo

aunque la información que ha llegado ha llegado gota a gota y cuando ha llegado

no hemos conocido un estudio real de las alternativas de pasante actualizado en el tiempo siempre se han remitido

es decir que no se han adaptado los estudios de las alternativas a pasantes al momento actual

su viabilidad social su plan de financiación y concertación con otras administraciones el panorama a veintiuno de marzo del dos mil trece y en relación con los tramos

se ha licitado estos dos tramos en junio se toma la decisión de licitarlos con carácter de urgencia cerrando anticipadamente el proyecto de obra civil

acabados de vías marquesinas y varios se licitan las obras sin disposición de créditos suficientes para cubrir la totalidad de las obras y como no se dispone de financiación

cuando se estiman que se necesitan ochenta millónes más para obras necesarias tales como la obra en la vía y superestructuras de lugaritz morlans la obra civil en el interior de las estaciones

equipos electromecánicos instalaciones eléctricas señalización ferroviaria

expropiaciones y la lista es más larga señor arriola es decir que faltan más de ochenta millónes de euros sin contar

no sea un túnel sin más que el gobierno del señor lópez no tenía crédito suficiente para su financiación y tampoco tenía acuerdo

para los ejercicios dos mil trece dos mil catorce dos mil quince y dos mil dieciséis para hacer un túnel

que ya sabían cuando licitaron que no podían pagar dónde estaban las líneas rojas en este departamento

pero la financiación más bien su falta siendo esencial no es la única denuncia que le hacemos al desarrollo de este proyecto

no se pueden iniciar las obras como antes se lo han recordado y de hecho no las inician en la fecha prevista que era el dieciséis de noviembre del año pasado porque no hay disposición de suelos

y no se han resuelto las alegaciones ni se han formalizado las actas de ocupación

no cuenta con autorización ambiental según la ley cuarenta y uno barra dos mil diez de protección de medio marino es perceptible esta autorización al discurrir bajo playa

antes del inicio de las obras que se encuentra pendiente de licitación

como no tenían medios no licitaron

se gastan más de uno millón de euros si no creo recordar mal un millón setecientos mil euros en cambiar

y no disponen de dinero para licitar la seguridad de los edificios las inspecciones de la seguridad de edificios cuando sabe usted que es

en la relación a las enmiendas presentadas por los otros grupos políticos el partido socialista insta al gobierno a que prosigan las actuaciones comprometidas y en particular se refiere a la pasante soterrada decirle que aunque quisiera este gobierno no podría porque los compromisos asumidos como usted ya sabe y como ya he relatado son irrealizables y sería de una gran irresponsabilidad continuar con esta obra

convenios que excepto el de donostia no se firmaron cuando ustedes gobernaron por cierto cuál ha sido el seguimiento del convenio firmado en donostia

que a su vez han supuesto modificación en el proyecto y me refiero a la eliminación del ataque de la concha que supondría demoras en el tiempo de ejecución

tampoco compartimos como es obvio la enmienda del partido popular por todo ello y

solicitamos al gobierno vasco desde la consideración

no es la más adecuada para dar respuesta sostenible a las necesidades reales de movilidad instamos a la resolución de las obras y contratos adjudicados

y la diputación foral de gipuzkoa ni cuentan con la financiación requerida para su ejecución integral mila esker eskerrik asko vaquero andrea

de caprichos y de chapuzas nada tenga por lo menos una cierta consideración a todo el trabajo que se ha desarrollado desde el departamento en el desarrollo de esta infraestructura un trabajo arduo en los tres años y medio

un trabajo que ha supuesto desarrollar los estudios informativos

los proyectos constructivos y llegar a adjudicar la obra al final de la pasada legislatura lo que supone la pasante soterrada insisto una obra clave y fundamental para la sostenibilidad

en el transporte ferroviario en gipuzkoa lo he dicho antes si esta obra no se hace el resto de actuaciones que puntualmente se puedan acometer

no serán más que cuestiones que sin duda serán beneficiosas para los usuarios

de viajeros en el ámbito de donostialdea seguiremos poniendo parches que no servirán para nada de verdad

de impulsar decididamente el transporte publico en el territorio no lo quieren ver

y en este caso están ustedes no acabo de entender por qué en contra de una infraestructura que es fundamental para

al territorio de gipuzkoa a seguir manteniendo unos niveles de infraestructura ferroviaria herederos del siglo diecinueve con apaños en el veinte en el veintiuno eso es lo que estamos haciendo con la decisión que se está adoptando por parte de este parlamento

me apena ciertamente que esto sea así pero lo digo hoy en este parlamento un error histórico con gipuzkoa estamos renunciando a impulsar una infraestructura estratégica fundamental para el futuro de nuestro territorio

me imagino que conscientemente en base a tomar una decisión que va a hipotecar definitivamente la solución del problema del transporte en gipuzkoa

voy a hacer una lectura de algunas afirmaciones que comparto

parlamentaria en juntas generales de gipuzkoa hay gente que tiene una visión equivocada de lo que es el proyecto de metro donostialdea

de euskotren en todo el área metropolitana que incluye ampliación de las líneas soterramiento y la construcción de una doble vía en todo el trazado que permita cruzarse los trenes y por tanto mejorar las frecuencias del servicio no es un metro solo para donostia es un ferrocarril metropolitano para que se pueda ir desde renteria a lasarte o

dignificar el topo porque es el transporte que utilizan todos los días miles miles de trabajadores y trabajadoras se ha demostrado que la única manera

y eso solo puede hacerse mejorando el transporte público y si además podemos hacerlo bajo tierra y ganar espacio urbano en superficie pues mejor que mejor

en juntas generales de gipuzkoa vemos muy claro que debemos dar

para dar una respuesta al problema de movilidad que padecemos y nos da igual la terminología o las palabras que se utilicen en este caso metro donostialdea está claro que este proyecto no se debe centrar solamente la zona de donostia

el transporte público rebeca ubera en juntas generales de gipuzkoa

en fin qué está pasando aquí por no decir que el partido nacionalista vasco está incumpliendo literalmente su programa electoral

en las elecciones al parlamento vasco incumpliendo literalmente su programa electoral que recogía impulso a la pasante

qué está pasando aquí y no hay razones económicas ni técnicas para que esto sea así y hay consignación presupuestaria en el gobierno lo he dicho ciento diez millónes en créditos de compromiso en el gobierno vasco hasta dos mil dieciséis cuarenta millónes en créditos de compromiso en euskal trenbide sarea hasta el dos mil quince y efectivamente se ha adjudicado

como suele ser habitual en muchas obras como suele ser habitual en muchas obras

repasamos muchas obras cómo se adjudica primero la obra civil y posteriormente se van adjudicando la superestructura

habitual y tenemos años por delante muchos años por delante para con un esfuerzo sostenido poder sacar adelante una infraestructura estratégica

por este parlamento por qué

mila esker presidente andrea uy brevemente la señora

solo las ventajas es verdad que es una infraestructura con

cualquier cosa de estas dimensiones que se ponen en marcha pero es que fíjese usted si hablaba de las desventajas que usted hablaba de las molestias que generaban las obras

como si no hubiera ninguna infraestructura que generaran molestias a los vecinos o a los comerciantes

no hubiéramos sido capaces de desarrollar ninguna infraestructura no solo ninguna infraestructura sino ningún equipamiento ni en esta tierra ni en ninguna otra

convenimos en eso que es una cuestión de modelo el problema está que su modelo es la nada

porque a mí me gustaría saber cual es el suyo lo sé lo intuyo

por eliminación es que dígame usted con qué están de acuerdo un solo proyecto guipuzcoano con el que estén de acuerdo y gobiernan ustedes en gipuzkoa

que quienes gobiernan paralizan suele ser la oposición la que pone palos en la ruedas una oposición malentendida la que intenta que el gobierno no funcione oiga en gipuzkoa tenemos un gobierno que se pone palos en las ruedas así mismo

uno que hayan impulsado ustedes más allá del puerta a puerta por supuesto y la imposición de las basuras en la calle un solo proyecto que eh bildu haya

ya no le digo hayan paralizado que esos todos son todos uno y ahora la inmensa sorpresa es que a esa labor de paralización se le suman estos señores

en gipuzkoa y entonces ya no es que quienes gobiernan paralicen todo

se suman a ustedes lo han conseguido han arrastrado a partido nacionalista vasco a esa actitud y a esa estrategia de parálisis en este caso de todo lo que suene a gipuzkoa porque

en san sebastián hay alcalde de bildu

hay diputado general de bildu evidentemente porque les han votado pero ustedes saben que podía haber sido de otra manera y la realidad es que dependía de estos señores

en bilbao y en bizkaia si hubiera dependido de estos señores nunca hubiera habido un alcalde en bilbao

lo que no sé es por qué en gipuzkoa tenemos que padecer esta cruz y por qué además ahora ustedes se suman

a esta actitud de parálisis a todo lo que suene guipuzcoano a todo

a progreso no lo entiendo señora baquero no lo entiendo porque ustedes hablan de hacer euskadi y no es cierto

pero si los mayores centralistas son ustedes alguien puede defender con un mínimo de criterio y me da igual que me acusen de ser provincianista

de verdad que alguien puede defender eso de verdad que existe un equilibrio en cuanto a infraestructuras entre las tres capitales vascas de verdad que defienden eso es que no me lo creo

conocen bilbao conocen san sebastián y conocen vitoria es que no aguanta la comparación territorialmente

no aguanta una comparación y esto es un verdadero problema porque encima no hay luz al final del túnel es que lo que viene es un tren en frente porque estos señores gobiernan y su proyecto es la nada

y eso es a lo que nos están ustedes condenando pero claro nos condenan a los guipuzcoanos

claro que somos parlamentarios vascos y tenemos que velar por el interés del conjunto de euskadi claro que sí

pues a lo mejor tiene que sacar un poco el genio y a lo mejor tiene que sacar también el sentido común y la responsabilidad y no

territorialmente hablando las infraestructuras en euskadi no admite una comparación y las tres capitales están absolutamente descompensadas

se empieza a estudiar en el año ochenta y nueve los metros de bilbao y de san sebastián y miren ustedes qué es bilbao hoy de lo cual me alegro y es para felicitarse y es

envidiable y miren ustedes lo que es san sebastián hoy y no es

y si ustedes defienden que san sebastián que donostialdea que gipuzkoa es una maravilla en cuanto a infraestructuras de transporte público es que no conocen ni san sebastián

mila esker señor semper lo que usted no conoce es el transporte público de gipuzkoa

porque sino no vendría a hacernos esas afirmaciones tan gratuitas no tengo intención de entrar en los debates de más gipuzkoa menos bizkaia más bizkaia menos gipuzkoa mi territorio es euskadi soy guipuzcoana

es verdad que el partido nacionalista vasco ha demostrado muchas dudas desde el inicio en lo referente a la pasante que el gobierno socialista planteó como pasante soterrada

nunca el gobierno socialista ha contestado y los datos están ahí y sino

parece que tenemos la intención de que todas las infraestructuras sea cual sea tengan que ser paralelas en todos los territorios en el territorio histórico de gipuzkoa en el territorio histórico de bizkaia en el de araba

de pasante ferroviaria para el partido socialista es el metro

consiste en ver qué infraestructuras de movilidad necesitan los ciudadanos de cada territorio y atender a las necesidades de movilidad de esos ciudadanos no hacer una infraestructura en sí sino una infraestructura

en eso consiste lo que nos ha faltado siempre es la viabilidad y el señor

al estudio de mil novecientos ochenta y nueve del gobierno vasco pero le quiero recordar que se desestimó

el que se hayan desestimado varios estudios no ha dependido del gobierno vasco ha dependido en muchas ocasiones de lo que ha dicho el alcalde de donostia en ese caso el señor odon elorza

a ello el señor arriola dice que sería un error histórico no culminar

no el metro donostialdea señor arriola a mí no me confunda la pasante soterrada no no posibilidades de pasantes hay muchas otra cosa es la pasante soterrada de la que estamos hablando

el responsable de que esta pasante soterrada se haya hecho tan mal

es usted usted que no ha dispuesto de crédito suficiente

sí señor arriola usted ha dicho hemos sacado a licitación

quien se ha visto que se saque a concurso la obra civil y que ni siquiera sea la obra civil

justo la adecuada al dinero del que dispongo casualidades de la vida cómo que no si los números dan

por favor usted ha licitado una obra civil sin tener en cuenta las vías y las superestructuras

en el interior de las estaciones los accesos y acabados de lugaritz morlans las instalaciones eléctricas la señalización ferroviaria el mobiliario las expropiaciones

hipotecando a futuro las inversiones del gobierno vasco eso es lo que ha hecho usted incluso no recogió esta pasante ferroviaria

desde el principio y para terminar decirle

recoge lo siguiente continuar con la metrización

desarrollos de nuevos desdoblamientos inversiones en estaciones

pero no con la chapuza y digo chapuza que usted ha hecho y teniendo en cuenta que ustedes en prensa están diciendo que el banco europeo nos ha concedido

una cantidad importante para hacer frente a esta inversión yo denunciar que no es cierto porque no ha habido solicitud formal por parte del gobierno vasco cuando ustedes gobernaban para esa financiación

mucho me temo que evidentemente si no hay una petición formal mucho menos habrá habido una contestación a parte de una conversación con la señora álvarez mila esker

señoras y señores hace algo menos de un año saltaron algunas alarmas sobre los recortes del gobierno de españa

algunos responsables políticos del territorio del partido popular

y presumieron de tener hilo directo con la ministra de fomento para afirmar que en foronda todo seguiría igual

se hacen públicos los recortes en diecinueve aeropuertos de españa con una reducción en el horario de funcionamiento hasta quedar en sesenta horas semanales para el aeropuerto de foronda a un aeropuerto que ya estaba herido en el transporte de viajeros

un golpe letal haciéndole perder competitividad

a partir de este recorte todo entraba en crisis los vuelos de pasajeros los vuelos de carga el aeroclub el transporte aéreo privado los puestos de trabajo los servicios ligados al aeropuerto y así se consumaba un conjunto de mentiras lanzadas desde algunas instituciones

de que estaban trabajando justamente para potenciar el aeropuerto desde entonces trabajadores del aeropuerto sindicatos partidos políticos la mayoría de ellos instituciones usuarios

y para el mantenimiento del horario de la actividad y de la plantilla y a medida que han pasado los meses todo ha ido a peor desde esa mayoría absoluta del partido popular en españa y desde esa desidia de los representantes del partido popular en álava

se ha reducido el horario se ha recortado la plantilla se ha impedido la actividad se ha hecho una publicidad nefasta se ha puesto todo en cuestión

de vuelos charter sobre la operatividad de los vuelos para emergencias sanitarias o con los sobrecostes fuera del horario

con lo que se pone en duda si el establecimiento de esos sobrecostes abusivos

aún más la posibilidad de vuelos desidia de los representantes del partido popular que lleva a que un parlamentario

que viene a esta cámara solo para defender a vitoria como es su alcalde no tenga ningún interés en estar presente en este debate foronda

fue el aeropuerto de españa que más creció en carga el veinticuatro por ciento después de madrid barcelona

qué pasó entre el treinta y uno de diciembre del año dos mil once con estos datos

en el ministerio de fomento para cargarse foronda ellos lo saben y ellos tienen que responder lo que los demás sí sabemos es que desde entonces hemos tenido la rocambolesca historia

que duró justo el eco de la campaña electoral justo el eco de las elecciones autonómicas parece que se cogió a vuelo

porque nunca se ha materializado porque nos opusimos a ello recabar recursos públicos para así financiar un transporte un tanto fantasma pero hay que reconocer que la compañía se prestó pasó

remontó el vuelo pero para no volver al aeropuerto de foronda también ha habido en este tiempo

y de ese vuelo fantasma incumplimientos de contratos cancelaciones de vuelos incapacidad para gestionar vuelos fuera del horario incapacidad del ministerio de fomento para dialogar y resolver con los representantes sindicales pérdida de oportunidades de vuelos

ya que el aeropuerto estaba cerrado facilidades eso sí a burgos para que aumentara su capacidad horaria y daremos la enhorabuena a los burgaleses y también facilidades a zaragoza para que potencien su aeropuerto y también la enhorabuena a los maños

trufadas de dificultades para el aeropuerto de foronda para el aeropuerto de vitoria que es el que se ha llevado la peor parte de toda esta reconversión

está haciendo el ministerio de fomento y por si todo esto no fuera suficiente también se ha planteado la eliminación

menos competitivo señoras y señores el gobierno de españa el ministerio de fomento no solo han despreciado los intereses de los alaveses sino que también

que ni el diputado general ni el alcalde ni el partido popular vasco en este asunto como en otros muchos pintan nada bien lo sabe

y el señor oyarzabal que no resolvieron nada en el ministerio aquel veintitrés de julio del año pasado porque aunque al día siguiente el día veinticuatro en un alarde de publicidad el diputado general de álava afirmó el aeropuerto no abriría todo el día pero que se atenderían

todas las necesidades que surgieran desde entonces

es que el aeropuerto de foronda es noticia porque deniega permisos para operar a dhl

autoriza el aterrizaje de varios aviones de gran tonelaje porque llena de incertidumbres y dificultades los vuelos de pasajeros

porque aunque después se llegara a arreglar este asunto el daño público ya estaba hecho con una publicidad que ha provocado

eco de ella que este es un aeropuerto en liquidación y en cierre y por lo tanto un aeropuerto con el que no se puede contar cuando se trata de planificar vuelos por todas las dificultades y negativas que en torno a él concita el ministerio de fomento y quienes están gestionando este aeropuerto

señoras y señores el potencial logístico del aeropuerto de foronda más los puertos vascos más el tren de alta velocidad

constituyen una oferta y un servicio de primer nivel para el país vasco pero hay que pelear por él hay que pelear porque

en un proceso por parte del ministerio de fomento de desmantelamiento que va más allá de lo que estamos hablando hoy aquí y que también afecta a otras infraestructuras y también afecta a otros servicios logísticos

hay que mantener el puesto de inspección fronterizo hay que mantener la plantilla que necesita

que sea competitivo de las características del de foronda por avanzar también

en que euskadi tenga un aeropuerto con tres terminales este es el objetivo de país que debiera de tener este parlamento en relación con sus infraestructuras

y para hacerlo hay que enfrentarse con medidas unilaterales de recortes del gobierno de españa que

sin sensibilidad económica y social y que incluso desvirtúan otros acuerdos como el de la financiación pactada por los servicios que

no es de recibo que se rompan acuerdos de manera unilateral que haya recortes y políticas que afectan al compromiso contraído las instituciones vascas y las instituciones del estado porque las competencias que tiene el estado

con lo que se acuerda en relación a esa financiación con el país vasco por estas razones y por muchas más los socialistas hemos traído esta iniciativa a esta cámara para que se pronuncie por el restablecimiento de la actividad de las veinticuatro horas

el puesto de inspección fronterizo y también para que se mantenga plantilla instalaciones servicios operatividad potenciación

del aeropuerto de foronda cada día que pasa es más evidente que todas las medidas que está tomando el ministerio de fomento y todas las dificultades de gestión añadidas

a la desaparición de toda la actividad por todo ello hoy es urgente por todo ello hoy la urgencia es parar esta política anti foronda del ministerio de fomento y para ello en el mes de diciembre

del mes de diciembre presentamos esta proposición no de ley una iniciativa que hoy cuenta con una enmienda transaccional acordada con el grupo nacionalistas vascos

la enmienda transaccional contiene los dos puntos reflejados

y otros dos del grupo nacionalista referidos al inicio de conversaciones la transferencia de la competencia aeroportuaria prevista en el estatuto de autonomía y a instar al gobierno de españa a constituir el comité de coordinación

la iniciativa socialista y espero que sea apoyada por esta cámara muchas gracias eskerrik asko prieto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal

gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios buenos días

el señor prieto el defensor de foronda

después de hundir foronda señor prieto la desidia a la que usted se refería

y la de su partido la culpa de esta situación es de su partido en el gobierno vasco no hicieron nada por foronda y en el gobierno de españa lo que hicieron fue hundir

las medidas que tomó el ministerio de fomento socialista y en el gobierno vasco como decía nada de nada solo palabrería e incumplimientos

yo tengo en primer lugar que decir que mi grupo así como las instituciones vascas en la que tenemos responsabilidades políticas y capacidad de actuación apuesta

por su desarrollo y continuidad por su impulso como infraestructura estratégica en el norte de españa y por dar los pasos necesarios para desde presupuestos y actuaciones públicas

las potencialidades de esta importante infraestructura de este importante aeropuerto que tiene los máximos medidas de seguridad y que también tiene una situación estratégica importante pronto tendremos un debate de presupuestos vascos

y sí que tendrá que ser ahí donde foronda tenga un protagonismo en su desarrollo y su futuro tengo que decir también que nuestras instituciones

esta misma semana se seguía refiriendo a la necesidad de seguir convenciendo a aena

y que tanto el ayuntamiento de vitoria eso hay que recordarlo como la diputación aportan fondos para tener vuelos y actividad de foronda algo que no hacen otras instituciones

que tiene tres puntos y que son muy claros en relación con nuestro compromiso con foronda

en el primer punto manifestar nuestro compromiso del parlamento con el futuro del aeropuerto de vitoria gasteiz e instar a las instituciones y al gobierno central a revisar y en su caso tomar las medidas oportunas que garanticen su viabilidad y su futuro ahí está la declaración

instábamos desde el parlamento al gobierno vasco a poner en marcha el comité de rutas de la comunidad autónoma vasca a fin de que junto con las diputaciones se tomen las decisiones necesarias de reparto de rutas entre los aeropuertos vascos que aseguren la viabilidad y eficiencia del aeropuerto de vitoria gasteiz y del resto de aeropuertos situados en la comunidad autónoma del país vasco esto ustedes no lo ha hecho hablaron mucho pero ustedes no hicieron esto

a establecer de manera urgente un convenio con la sociedad via la sociedad

de aportar fondos para la atracción y promoción de vuelos de pasajeros en el aeropuerto de vitoria gasteiz cuestión que el gobierno vasco tampoco nunca ha hecho y que nosotros reclamamos y exigimos

una enmienda de totalidad que hace una declaración importante y además trata de poner a trabajar a las instituciones y al propio gobierno vasco que tenemos que decirlo claro de nuevo nunca ha prestado

de totalidad buscan una implicación efectiva del gobierno vasco con foronda cuestión pendiente y que el ejecutivo tendrá que reconocer implicándose en el futuro del aeropuerto

el gobierno vasco no puede escaparse y debe de trabajar para asegurar trabajo y destinos al aeropuerto como lo hacen como lo han hecho otros gobiernos autonómicos y vuelvo a repetir el gobierno

no hizo como gobiernos como el de cantabria o el de aragón cuestiones importantes en relación con el desarrollo de sus aeropuertos ahí fracasaron señor prieto y usted lo tiene que reconocer y si no no dirá la verdad como ya se ha dicho aena entiende y eso lo ha dicho

y desde luego también considera que el pif puede seguir existiendo

reafirma su deseo de que foronda acoja vuelos del horario actual y eso lo decían claramente bueno el ministerio

a foronda un aeropuerto estratégico y eso lo consideran y están tomando medidas están trabajando

posibilidad de relanzar foronda eso está ahí y en relación con el punto de inspección fronteriza el pif no se ha cancelado

si se necesita se va a tener yo tengo que hacer una referencia en relación con esta cuestión

la dirección general de coordinación de la administración periférica del estado realizó durante el primer semestre de dos mil doce un análisis de actividad de las instalaciones fronterizas en las que desempeñan su actividad los servicios de inspección sanitaria

y de agricultura de las delegaciones del gobierno el objetivo de su análisis fue evaluar la actividad de los puestos de inspección

existentes en españa veintiuno en aeropuertos veintiuno en puertos

entre las que se encuentra la correspondiente al aeropuerto de foronda habían registrado un nivel de actividad en los últimos cinco años

que su mantenimiento requiere y como dato ilustrativo señalaba que españa es de lejos e incluso tras la suspensión de los trece referidos el país que más pif tiene de la unión europea alemania

quitando incluso suspendiendo esos trece seguían los que

alimentaria y veterinaria de la comisión europea que tuvo lugar en junio del año pasado y que debido a sus recomendaciones ha provocado la comunicación

y dos puertos esta suspensión de todas maneras puede ser revocada con una simple comunicación por parte de las autoridades españolas en cuanto

nada de cancelación ni de neutralización ni de desaparición del puesto suspensión y eso es lo que tiene que pasar que haya más vuelos y que haya más vuelos de carga

con esas características en cualquier caso con respecto a foronda aunque temporalmente hayan quedado suspendidas las instalaciones para el control de animales vivos y productos de origen animal continúa funcionando

para el control fitosanitario de productos vegetales igualmente se mantiene la posibilidad de la exportación de mercancías sujetas a control sanitario

las cuestiones a las que usted se refería sino la cuestión concreta cabe señalar que

el pasado mes el delegado del gobierno acompañado por el presidente de la cámara de comercio por el gerente de la sociedad de promoción del aeropuerto

de revertir la situación producida concretamente se reunieron con la dirección

dirección general de sanidad de producción agraria con la dirección general de aena con la dirección general de salud pública

esos responsables institucionales fue la misma disposición a modificar la decisión tomada con respecto al pif de foronda en el momento en que se asegure un nivel de actividad carguera suficiente

en la actualidad a esta instalación en consecuencia

de los limitados recursos máxime en tiempos de crisis que atravesamos no obstante esta dolorosa decisión nadie entendería que se dilapidaran

en una situación actual puede modificarse si a través de las gestiones realizadas por vía y las que puedan realizar todas las demás instituciones vuelvo

sufridas en los últimos años bueno y este planteamiento

muy especial vuelvo a decirlo el gobierno vasco y así lo planteamos en nuestra enmienda

que fije destinos al aeropuerto vitoriano y la aportación de fondos del gobierno vasco había para atraer nuevos destinos de pasajeros y carga

efectiva cuestión en la que otras instituciones como la diputación y el ayuntamiento de vitoria ya están trabajando el gobierno vasco no ha movido nunca un dedo por foronda

de la gestión unificada de los aeropuertos vascos como a elemento a estudiar

porque señoras y señores parlamentarios una cosa es cierta cambios y reformas tiene que haber el déficit

con el gobierno socialista de españa la plantilla se disparó un setenta por ciento además

dos mil ocho y dos mil nueve todavía el personal seguía creciendo esos mismos años es decir actuación irresponsable del gobierno de españa entre los años dos mil cinco y dos mil once esa actuación irresponsable hizo

y que hoy foronda tenga los problemas que tiene y que otros que no son un gobierno socialista tendrán que resolver muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

presidenta nosotros estábamos bastante de acuerdo con la iniciativa original y también estamos de acuerdo con algunas

el señor barrio más allá del cruce de acusaciones entre unos y otros

desde fuera podríamos realizar a cada uno de ellos como representantes de distintos partidos políticos que han tenido responsabilidad en el presente y en el futuro del aeropuerto

sí que nosotros lo que hemos querido hacer ha sido presentar una enmienda de totalidad

original y que en este caso pretende introducir un asunto que en este parlamento se trató en una ocasión en una comisión

encima de la mesa para al menos observar qué es lo que ustedes piensan sobre la materia por lo tanto nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad que tiene básicamente

esta primera parte era que este parlamento instara al gobierno de españa para que a través de aena aeropuertos por un lado paralice

y plantee uno nuevo con una plantilla capaz de mantenerlo operativo las veinticuatro horas del día los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año y por otro lado que estudie las diferentes posibilidades de reimplantación del horario operativo de veinticuatro horas en este aeropuerto y esta enmienda de totalidad efectivamente

proponemos que este parlamento vasco inste al gobierno de españa al gobierno vasco a la diputación foral de álava

abandonar el proyecto de soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por vitoria cosa que ya

hace un par de años si no recuerdo mal y recibió el voto contrario del resto de grupos y por otro lado a estudiar como alternativa

inviable en la actualidad y en el futuro también que estudie la posibilidad de establecer el paso en superficie del tav por las cercanías del aeropuerto de foronda de ubicar

el trazado del tranvía vitoriano desde la estación de ibaiondo hasta foronda para comunicar la estación intermodal con el centro de la ciudad

los portavoces que me han precedido han planteado a nosotros sí que nos gustaría recordar que el ere de extinción que planteó aena para

del aeropuerto de foronda supone que si posteriormente y ante un incremento de vuelos

el horario de veinticuatro horas esto sería imposible pues no habría trabajadores suficientes para asegurar su funcionamiento

comité de empresa lo cierto es que reconoce estar dispuesto a que la plantilla pueda disminuir pero no de una forma tan drástica y de una forma irreversible y yo

por qué no se ha optado por un ere temporal reduciendo por ejemplo la jornada laboral de toda la plantilla que sea necesaria por si al cabo de un tiempo y en jornada completa se decide reimplantar el horario

la situación a la anteriormente existente todas estas cuestiones esperamos que se nos aclaren en las comparecencias que hemos pedido ante la comisión

comparecencia de la directora del aeropuerto de vitoria para que explique su gestión

via promoción del aeropuerto de vitoria para que explique su gestión respecto al aeropuerto

para que expliquen su postura y

podamos escucharles por lo tanto eso respecto a la primera parte de esta enmienda de totalidad y respecto a la segunda parte de la enmienda

sí tenemos ideas sobre proyectos que consideramos que son

y que además pensamos permitirían relanzar o apoyar el aeropuerto de foronda ideas que por otro lado los representantes de los trabajadores de foronda parece que ven con buenos ojos entro en ello según los datos que se manejan el soterramiento del tav a su paso por vitoria

exigirá una ingente cantidad de dinero se manejan cifras superiores a los quinientos millónes de euros

repartidos entre el ministerio de fomento el gobierno vasco la diputación foral de álava y el ayuntamiento de vitoria gasteiz

requiere e incluso más allá de la situación económica en la que nos encontramos conviene

a las necesidades de los ciudadanos y analizado lo que se pretende y las alternativas existentes en nuestra opinión es evidente que no es en absoluto una obra imprescindible el soterramiento no es en absoluto imprescindible puesto que existen alternativas mucho menos costosas y gravosas y mucho más razonables y sostenibles además como ya he dicho en el punto anterior nos encontramos en una época

a la que pretendemos dejar atrás un tiempo en el que los representantes públicos debemos hacer entre todos un uso comedido y austero de los dineros públicos lo decía también en el punto anterior en españa se han construido infraestructuras por encima de nuestras posibilidades

se situá por encima de nuestras posibilidades y hay otras como pueden ser el puerto exterior de pasajes creo que ha llegado el momento de replantearnos todas estas obras

infraestructuras realmente necesarias o defender determinados proyectos que sí piensan en el bienestar de los ciudadanos y desde luego para poder garantizar más estado del bienestar ya en el año mil novecientos noventa y siete y según respuesta a nuestra

junto al aeropuerto de foronda existía una alternativa a foronda en un estudio informativo del ministerio de fomento pero parece que decayó pues al parecer no era lo suficientemente caro incluso ya hay voces destacadas en el partido

el señor de andrés diputado general de álava el señor alfonso alonso ex alcalde de vitoria presidente del pp en álava y portavoz en el congreso de los diputados

hasta foronda y también hay voces en el actual gobierno vasco concretamente la de la consejera de medio ambiente y política territorial que abogan por una conexión ferroviaria

de jundiz en fin qué mejor apoyo al aeropuerto de foronda

en el propio aeropuerto por tanto ante la rareza de que en una ciudad situada en el centro de una llanada se pretende impulsar con el dinero de los ciudadanos el innecesario soterramiento del tav ante el incremento incesante de los importes a pagar por esta infraestructura cada vez que se pública una cifra

ante la dependencia de la especulación urbanística en más de un veinte por ciento del importe del proyecto

económicas actuales de las administraciones públicas y también para potenciar el aeropuerto de foronda nosotros lo que proponemos es lo que dice en su segunda parte esa enmienda de totalidad proponemos instar al gobierno de españa al gobierno vasco a la diputación foral de álava

por un lado como decía antes abandonar el proyecto de soterramiento y por otro lado estudiar como alternativa

la posibilidad de establecer el paso en superficie del tav por las cercanías

y de prolongar el trazado del tranvía vitoriano desde la estación de ibaiondo hasta foronda para comunicar la estación intermodal con el centro de la ciudad en conclusión

apoyo al aeropuerto de foronda y por otro lado propuesta concreta una propuesta concreta que pensamos es buena para los ciudadanos alaveses que es buena para los ciudadanos vascos que es razonable que es menos costosa que el soterramiento y que además insisto serviría para ayudar a que el aeropuerto de foronda pueda tener

vaya en primer lugar el apoyo solidario de nuestro grupo hacia los trabajadores afectados y nuestro más ferviente deseo de que finalmente se alcance un acuerdo entre la dirección y los trabajadores orientado a la recolocación de todos ellos y a la no existencia

ya se ha explicado por el proponente de la iniciativa el señor prieto las principales afecciones que

nos genera a los alaveses en el aeropuerto de foronda y

al respecto que el objetivo político de nuestro grupo ha sido y es conseguir que el aeropuerto de foronda

el puesto de inspección fronteriza que se pretende suspender ahora bien inmediatamente a continuación hay que decir que el aeropuerto de foronda es una infraestructura de titularidad estatal que gestiona aena adscrita al miniesterio fomento para el ejercicio de la competencia aeroportuaria estatal y la competencia

desde esta tribuna es el conjunto de poderes atribuciones

que es la cuota de poder que se asigna a cada administración pero también y esto es lo que quiero remarcar en el día de hoy las responsabilidades que se derivan de la actuación administrativa del ente

los aeropuertos juegan un papel importante en el sistema de transportes de una sociedad moderna y urbanizada como la asistente en euskadi densamente poblada y con una

economicamente muy activa son una herramienta fundamental para que podamos competir economicamente con otras regiones y otros países

por eso en su día presentamos una enmienda de totalidad a la iniciativa del grupo socialista en la que proponíamos además de apoyar obviamente la

la transferencia de la competenecia en materia aeroportuaria prevista en el artículo

hace treinta y cuatro años casi y que al día de hoy se haya sin materializar

el gobierno español unas veces gobernada por el partido popular y otras por el partido socialista ha realizado también desde la aprobación

decidiendo inversiones estableciendo las tasas aplicadas a cada aeropuerto

que hoy nos ocupan la asignación de franjas horarias para operaciones de las aeronaves y para las relaciones entre las diferentes compañías aéreas que operan en el aeropuerto

el actual sistema aeroportuario español es una potente herramienta de control político

puesto que mediante su funcionamiento en red añadida a política de franjas horarias y tasas seguida por

el papel que cada aeropuerto juega en el sistema de transporte y para jerarquizarlos entre ellos es decir cuál de ellos se considera prioritario frente a otros

lo que a su vez conlleva inexorablemente una jerarquía entre las áreas urbanas en las que se hayan y condiciona evidentemente la relación entre estas áreas urbanas en resumen la gestión en red y el mecanismo de caja única practicado

posibilita la asistencia de subsidios cruzados entre los aeropuertos define el papel específico de cada aeropuerto

etcétera jerarquiza las áreas urbanas en todo el estado y es un instrumento de primera magnitud

puesto de inspección fronteriza decir

para el control sanitario y productos de animales vivos o embasados que procedan de ellos

decir que foronda ha sido el mayor puerto pesquero del estado como dicen en la actualidad los trabajadores del aeropuerto ahora con la reducción

si solo operamos doce horas y si no hay pif no habrá pescado

por tanto estamos en una situación sin salida señor barrio

no opera de un día para otro en bruselas hace falta su tiempo por tanto no somos tan optimistas tal como lo plantea usted creemos que

es más complicado reabrirlo nuevamente y creo que no es justo tampoco señor barrio decir que el gobierno vasco no se ha implicado en la promoción del aeropuerto de foronda

por no remontarnos a épocas anteriores solamente en el último presupuesto

se destinan algunas cantidades y desde luego participa en el capital social de via con el veinticinco por ciento si mal no estoy informado señor barrio por tanto creo que es injusta su afirmación

aspectos relativos a los puestos de interés general a supresión de foronda como

porque no alcanzamos a comprender por las cuales en euskadi los tres aeropuertos tienen esta denominación nos parece ininteligible no obstante

en el proceso de negociación de las transferencias pendientes que debe ir de la mano por tanto hemos aceptado su eliminación

como digo una de las competencias pendientes de materialización tras treinta y cuatro años de después de la aprobación del estatuto de autonomía y como estamos viendo no se trata en palabras utilizadas ayer mismo por el consejero erkoreka en su comparecencia de una comparecencia cualquiera

y para la creación de riqueza económica en su territorio para nuestro grupo político el pleno desarrollo estatutario es un objetivo prioritario por eso lo hemos mantenido finalmente como ha dicho el señor prieto mantenemos la última de nuestras propuestas de la enmienda a que mientras

de recursos bienes para el ejercicio de la competencia se constituya el comité de coordinación aeroportuaria

con esta enmienda que hemos alcanzado un acuerdo con el grupo socialista les animaría al resto de grupos a que

que no va contra nadie sino que va en beneficio de todos los alaveses por eso demandando su apoyo espero el siguiente turno para completar algunas de las cosas que aquí se pueden hacer eskerrik asko